barrio baroja carmelo becerra carollo josé ramón

castelo de sa alexia corcuera leunda susana damborenea basterrechea antonio

de andrés guerra javier de bengoechea estrade juana egibar artola joseba

estarrona elizondo josu etxebarrieta legrand oihana

kortajarena ibañez nerea larrion ruiz de gauna miren

latxaga ugartemendia david lopez de arroyabe saez de maturana eva

tellería orriols luis javier ubera aranzeta rebeka

urkullu renteria iñigo blanco de angulo eva

baina gure nahia ere bada ser elegido lehendakari de euskadi es el máximo honor lo agradezco ante la sociedad vasca

en este parlamento solo tengo palabras de agradecimiento gracias a esta cámara de la que salgo elegido lehendakari

al partido socialista de euskadi que reeditando la experiencia de hace ochenta años y de hace treinta años ha decidido compartir programa y gobierno

consejeras y consejeros todos sus equipos habéis dado lo mejor siempre y en todo momento por nuestro país

apoyo con toda humildad reconozco que el diálogo y el acuerdo van a ser imprescindibles esta legislatura euskadi es una sociedad plural y la colaboración forma parte de nuestra cultura hoy reafirmo el compromiso con un proyecto de futuro compartido para euskadi

garantizando cohesión solidaridad e integración social un proyecto basado en la colaboración nuestra prioridad es y crear más y mejor empleo ayudar a crear más y mejor empleo garantizar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales

acordar un nuevo pacto estatutario de futuro para euskadi afrontamos cuatro años fundamentales

hemos presentado un programa completo y concreto al servicio de toda la sociedad vasca comprometo cumplir fielmente nuestro mandato nuestro programa